no quiero comenzar mi intervención sin recordar que hoy es el día del orgullo lgtbiq más

en euskadi concretamente en bilbao sin duda un acto de valentía en aquellos tiempos en los que la dictadura estaba muy reciente

avances considerables todavía hoy queda mucho camino por andar son muchos años de luchas en las calles por los derechos y las libertades y hoy quiero poner en valor la lucha de todas esas personas que de forma individual

para reivindicar y defender nuestros derechos y también

es esta la lucha la que genera los avances en igualdad y libertad y no la mercantilización de nuestras identidades

porque fueron somos porque somos serán comenzamos hace un año y medio que nuestro grupo

cuya inadecuación de los tiempos y necesidades actuales es más que evidente esta proposición recogía las líneas de nuestro programa electoral

mucho como todas y todos sabemos presentamos un articulado básico para una reforma de la ley que pudiera completarse antes de terminar esta legislatura

la cual en la legislatura anterior no había realizado ningún progreso queda claro por tanto el compromiso de nuestro grupo parlamentario elkarrekin podemos

el trabajo que hemos realizado en la ponencia también es una muestra del mismo pese a que no fuera a nuestro entender la manera más eficaz de abordar la cuestión desde entonces hemos debatido mucho sobre e i te be y los graves problemas que afronta en la ponencia

y hemos aprobado algunas iniciativas sobre la falta de neutralidad e independencia de los informativos que ponen en evidencia el malestar de la mayoría de esta cámara

un tema que no es menor puesto que hablamos del cumplimiento de la función de servicio público de nuestra radio televisión pública algo que como veremos

vasca y que a día de hoy e i te be no garantiza desde el inicio de la legislatura en todas las ocasiones en las que la directora de e i te be ha acudido a la comisión de control ha quedado más que probado que carece de proyecto no solo eso ha quedado demostrado

ni siquiera tiene ninguna voluntad de rendir cuentas y cumplir con el mandato de este parlamento me refiero a su negativa a traer un plan estratégico para e i te be tal y como se le solicitaba hacía siete meses siete meses siete folios

elaborar ninguna estrategia una dirección por tanto quedó en evidencia que confiesa su incapacidad de elaborar

la del cinco de marzo nos presentó la evaluación del último plan estratégico que ha tenido e i te be una evaluación autocomplaciente carente de indicadores

cuya conclusión fundamental era que e i te be cumplió sus objetivos curioso a pesar de que está bajo mínimos históricos en audiencias en otra de sus comparecencias

la propia dirección a sí misma algo muy alejado del procedimiento evaluador mínimamente serio y presentable además de inaudito cualquier persona puede entender que

de independencia y de rigor algo que habitualmente se garantiza por medio de agentes externos

y buena gobernanza de los que tan lejos está e i te be como en otras ocasiones la directora general se negó a contestar la mayoría

y especialmente las que le realizó mi grupo parlamentario elkarrekin podemos una falta de respeto de nuevo a nuestro grupo y a la ciudadanía vasca una falta de transparencia

por ley además de ello la actual dirección tampoco ha sido capaz de explicar los criterios de adjudicación a productoras en la elaboración de sus parrillas televisivas bueno en realidad sí que nos explicó algo el director de etb alguna

yo creo que sin querer y venía más o menos a ratificar el hecho de que estas adjudicaciones son del todo arbitrarias creo que aquí sí puedo emplear esa expresión de a dedo sin que nadie

arbitrarias opacas sin un proceso público y contrastable en base a criterios objetivos de puntuación de los proyectos que se presentan

de adjudicaciones a una serie concreta de productoras y la concesión del servicio público a las mismas en lo que se refiere a determinados programas que hacen información política

de facto de una parte destacable de los programas informativos tampoco en aquella comisión de control se respondieron a las preguntas formuladas por parte de nuestro grupo una más

a determinadas productoras que tuvieron vínculos con miembros de la actual dirección siguen sin aclararse opacidad falta de transparencia y de nuevo silencio a las preguntas de nuestro grupo parlamentario a esta falta absoluta de remisión de cuentas se suma el hecho de que la actual dirección del ente continua con una política de contratación que ha supuesto de decenas de miles de euros decenas de miles de euros como consecuencia de fraudes de ley en la contratación inspecciones de la tesorería general de la seguridad social y minutas de abogados

de euros perdidos de dinero público además de estas pérdidas económicas es injustificable que e i te be infrinja la legislación laboral y fomente el fraude y condiciones no dignas de trabajo algo que volvió a plantearse en este pleno recientemente cuando aprobamos por mayoría solicitar a e i te be que lleve al tribunal superior de justicia

a la audiencia nacional los conflictos colectivos y a toda esta nefasta gestión se suma que nuestra radio televisión pública vasca ignora

e invisibiliza al cincuenta por ciento de la población ignora

e invisibiliza a las mujeres y además incumple la ley

su artículo tres los principios generales y qué principios generales incumple

no tenemos el mismo espacio que ellos así que incumple incumple con la igualdad de oportunidades de todas es sabido que no hay un solo programa en e i te be no hay un solo programa en e i te be en el que las voces de las mujeres estén igual de representadas que las de los hombres

todas tienen una sobrerrepresentación masculina así que incumple incumple con el respeto a la diversidad y a la diferencia incumple

la integración de la perspectiva de género incumple incumple con la representación equilibrada e i te be incumple con el cincuenta por ciento de la población

voy concluyendo esta semana hemos conocido los datos del sociómetro sobre e i te be que encargó la ponencia con las aportaciones de cada uno de los grupos en la elaboración del cuestionario

aportamos un número significativo de enmiendas y propuestas para que luego no digan que no trabajamos en la ponencia como en repetidas ocasiones hemos oído en este parlamento que muchas de nuestras afirmaciones y análisis eran solo valoraciones

qué cosas tiene la vida viene a corroborar muchas de estas y a reafirmar que la ciudadanía vasca pide cambios importantes en e i te be a modo de resumen voy a decir las cuestiones principales que nos deja el sociómetro e i te be

nadie se sorprende verdad e i te be no refleja de forma adecuada la pluralidad tampoco nos sorprendemos con esto verdad e i te be no cumple con la función de servicio público otra más la mayoría de las personas preguntadas prefiere que la tarea de control la realice un organismo independiente

la mayoría de las personas preguntadas quiere que la elección de la dirección general de e i te be la realice un órgano en el que estén representados la sociedad civil los partidos

y las profesionales tanto de e i te be como del sector y otro dato que es muy curioso que merece la pena que nos paremos a reflexionar todas y todos sobre él un cuarenta por ciento de las personas encuestadas no sabe no contesta sobre la gestión de la dirección de e i te be solo es como he dicho un resumen

la réplica sobre alguna de las otras cuestiones que se han abordado ha llegado por tanto el momento los partidos de esta cámara asumamos nuestra responsabilidad puesto que tenemos y la debemos ejercer de poco sirve lamentarse si cuando podemos hacer algo para cambiar

pedir hoy el voto favorable para esta iniciativa porque lo que hoy traemos aquí es la posibilidad de mejorar la prestación de servicio público por parte de e i te be y responder a las demandas de la ciudadanía y de las personas trabajadoras para acabar hacemos hoy una invitación clara y comprometida

buscar una persona de consenso que pueda asumir de forma inmediata la dirección de e i te be hasta que concluyan los trabajos de la ponencia y se haya producido el cambio legislativo

que asuma como tareas inmediatas garantizar una información plural imparcial y objetiva definir la plantilla estructural cambiar la nefasta política de personal y dar los pasos necesarios para que los procedimientos de selección de cargos directivos se hagan en base a los principios de igualdad de oportunidades
y carrera profesional besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arana

buenas tardes gracias señora presidenta buenas tardes a todos y a todas

sobre la radio televisión pública vasca lo hacemos todas las semanas los lunes en la ponencia de reforma y lo hacemos casi todos los jueves en el pleno

todos los jueves no tiene ningún problema en abordar de forma

que ha mencionado la señora arana que están relacionadas pero que no es lo que hoy sometemos a votación hoy lo que sometemos a votación es la petición de cese de la directora de la radio y televisión pública vasca no un nombramiento interino ni la mejora

público al menos eso no es lo que pone aunque esté relacionado en la proposición no de ley que debatimos todo este recorrido se lo voy a volver a decir aunque siento ser reiterativa ya lo hicimos la legislatura pasada se hizo

se debatió sobre la falta de pluralidad se debatió sobre el modelo de contrataciones se debatió sobre la neutralidad se debatió también sobre la mala gestión se debatió sobre la audiencia se pidió el cese se pidió la dimisión todo ese recorrido

en la legislatura anterior y algunas de esas batallas se ganaron pero finalmente lo que nosotros nos parece más importante que es abordar la reforma integral de la radio y televisión pública vasca no fue posible

y es un trabajo que yo sí creo que estamos realizando en la ponencia de reforma integral se ha hablado de una ponencia fallida y se dice que tenemos o la utilizamos para esconder a maite iturbe debajo de la ponencia yo quiero decir que

que están compareciendo en la ponencia y que con rigurosidad y responsabilidad están ofreciéndonos propuestas para la mejora de e i te be que queremos afrontar

por ejemplo a los sindicatos que están llamados en breve que esa ponencia solo sirve para eso no lo pienso y así lo digo como tampoco pienso y así lo digo que los grupos políticos entre ellos el de la proponente y que ha defendido la proposición

no es cierto en la ponencia se están estableciendo propuestas tanto para el modelo participativo como

para poner negro sobre blanco cuáles son aquellas que de manera integral afrontar esa mejora de servicio público esa mejor gobernanza esa mejor financiación y esa e i te be en la que todos y todas nos sintamos representados es algo conocido por los que nos sentamos aquí por los que se sentaban y las que se sentaban en la anterior legislatura que nosotros no compartimos ni apoyamos a la actual de e i te be y que mantenemos unas discrepancias con la misma mantenemos unas discrepancias que hemos dicho en todos y cada uno de los debates que se han producido en el pleno

y en la ponencia el problema es cómo afrontar esos problemas nosotros creemos como se acordó

anterior por el partido popular eh bildu y el partido socialista que esto tenía que afrontarse

una propuesta por la señora llanos del grupo popular y en eso estamos trabajando es algo

y después se sumó también elkarrekin podemos y en ese camino seguiremos los y las socialistas porque es la única alternativa que tenemos quienes creemos

otra forma de gobernanza otra forma de garantizar la pluralidad y la independencia de los contenidos de la radio y televisión pública vasca otra forma de garantizar las oportunidades reales para que los y las profesionales de la casa asuman nuevas responsabilidades

audiovisual otra forma de llevar la política de contrataciones de mejorar

y de audiencia la gestión de e i te be y hasta la semana pasada creíamos que era lo que habíamos entendido una amplia mayoría del parlamento porque hasta la semana pasada

con escritos registrados diciendo a la dirección lo que considerábamos que debía de hacerse

después algo paso para que alguno de los grupos o varios ya veremos cómo se desarrolla la votación cambiara de opinión

es sí se produce efectivamente la aprobación de la proposición y se pide el cese al gobierno de la actual directora de e i te be es qué hacemos los grupos qué le décimos

que haga qué les décimos a aquellos que no comparten por ejemplo el partido nacionalista vasco que esa directora no es la adecuada para la actual radio y televisión pública vasca qué les décimos cómo lo hacemos cómo lo hacemos

a comparecer en la ponencia muchas gracias por nada muchas gracias por nada

esperamos a que se cumpla o no se cumpla esa proposición no de ley

sabemos lo que sucede que la pelota está en el tejado del gobierno lo vuelvo a repetir

nada nuevo nosotros no compartimos pero nuestro socio de gobierno sí y mientras no nos pongamos de acuerdo

y siga en vigor una ley que diga que la propuesta de designación es del gobierno

y con esto y como esto formo parte de las conversaciones de noviembre de dos mil dieciséis el acuerdo al que llegamos con el partido nacionalista vasco

se incorporara a la defensa esa reforma integral y

que se está haciendo y yo creo que ese es el trabajo que se está cumpliendo se trataba de no cambiar a las personas sino de cambiar todo el modelo de la radio y televisión

el grupo socialista entiende que desde la dirección se hayan dado motivos para pensar que está muy tranquilos muchas otras han hecho alarde de una autocomplacencia incomprensible con la realidad se sortean las solicitudes de explicaciones sobre lo que hacen y que incluso muchas veces

ni compromisos es verdad que hay veces razones para pensarlo y también es verdad que lo hemos denunciado y lo hemos dicho en los distintos órganos tanto en los que

pero ante la situación a nuestro entender la respuesta oportuna sigue siendo la misma que les he dicho ofrecer alternativas que sean realistas y que se puedan llevar a la práctica si alguien sale de este pleno convenciendo al pnv de una cosa distinta a la que piensa hablamos

pero si no consiguen convencerles si no consiguen convencerles como hasta ahora no se les ha convencido tendremos que ir pensando en el mañana y el grupo socialista es en lo que estaba pensando en lo que ha pensado cuando ha presentado la enmienda

nuestro único compromiso es con la reforma integral de arriba a abajo y desde los cimientos por conseguir que la dirección sea designada por una mayoría cualificada

hacia el gobierno de turno sea este el que sea una gestión con mayor transparencia con contratos programas que sean visados por este parlamento

una e i te be con procedimientos de formación continua que inviten a los y las profesionales a adquirir nuevos perfiles y nuevas responsabilidades nuestro compromiso

audiovisual en el que la ciudadanía toda ella lo sienta como propio donde nadie se sienta excluido o excluida

de una forma u otra un servicio público en definitiva que garantice los derechos de los vascos y las vascas a tener una información

unos contenidos audiovisuales que se puedan ver en cualquier lugar del mundo que nos proyecten como una sociedad moderna

que compita en las nuevas formas de ver televisión fuera de los salones de casa

y ese compromiso sigue antes y después de la votación de esta proposición no de ley y seguimos tendiendo la mano a todos y a todas las que tengan un proyecto compatible con este compromiso para seguir trabajando en la reforma integral para seguir terminando esos trabajos previos a la toma de decisiones que es la que dará respuesta de verdad a todas las batallas políticas parciales que estamos librando pleno a pleno

porque es la única batalla que puede ganarse la de conseguir mejorar el servicio público y para eso no caben

sentarse y poner encima de la mesa negro sobre blanco

que queremos para mejorarlo como servicio y eso no se soluciona únicamente con una medida parcial y la proponente el grupo proponente

esa capacidad de dar ese servicio audiovisual público es el que nos permite una serie de garantías como el acceso universal la cohesión social el fomentar y el preservar la diversidad cultural lingüística funcional social

de nuestros valores singulares y también de nuestras industrias culturales

del año ochenta y dos nos habla de que

son medio fundamental de cooperación con nuestro sistema educativo y con el fomento y difusión de la cultura vasca teniendo muy presente el desarrollo y el fomento del euskera

hoy aquí y en los trabajos que rigen la ponencia también baina esango nuke ere hogeita hamabost urte pasa dira

lasai soseguz eta tentuz egiteko tenemos un contrato programa vigente

tenemos los trabajos en marcha de la ponencia para la reforma integral de e i te be como se ha dicho aquí tenemos estamos trabajando de manera constructiva

con la voluntad del trabajo de los grupos hemos ido llegando a acuerdos

obteniendo resultados sin ir más lejos el lunes pasado conocimos el sociometro que había sido encargado

a un amplio grupo de profesionales de profesores de catedráticos de la upv también

de prospección sociológica y esos resultados que la señora arana lee de una manera

particular y especial tal vez sea porque por unos problemas de salud no pudo venir a la ponencia y entonces no pudo

no escuchó las explicaciones de los responsables del estudio

pero efectivamente el sociometro nos dice que e i te be tiene una buena

además en los aspectos que nos preocupan en fiabilidad en pluralidad y en independencia de los medios en euskadi la mayoría de la población considera que los medios en euskadi

en cualquier caso estamos convencidos de que tenemos margen de mejora lo he dicho estamos dispuestos a hacer autocritica creemos que hay cosas que mejorar creemos que hay cosas que cambiar por eso estamos inmersos en la ponencia de reforma integral de e i te be

con esa ponencia y por eso estamos trabajando de manera constructiva haciendo propuestas haciendo trabajos colaborando cediendo

en los que es necesario igual que el resto de los grupos y empezamos insisto empezamos a ver los frutos

diferentes expertos por la ponencia los expertos nos están poniendo el foco en otras cosas diferentes que en quién es en este momento la persona al cargo de la dirección de e i te be señora arana

el foco está en afrontar los retos en afrontar los retos digitales en atraer a nuestros jóvenes en saber cómo tenemos que acertar con las programaciones

incorporarnos en este mundo cambiante en el que nos ha tocado vivir eso es lo que nos están diciendo ningún experto nos está poniendo el foco donde usted lo está poniendo y en otro debate que tuvimos

cámara también en este plenario que se suelen repetir le decía también a usted señora arana en palabras de fuller que no

demoler modelos si no tienes un modelo alternativo hay que construir un nuevo modelo alternativo

nos va a hacer dejar obsoleto el anterior y lo cambiaremos pero el cambio vendrá de la construcción del nuevo modelo

no de la demolición incontrolada de lo que hay creo que es muy poco responsable

decir que todo va mal el decir

un servicio audiovisual público que merezca la pena creo que ha sido el trabajo de muchas décadas el trabajo de muchos profesionales el trabajo de muchas personas

que tiene sus carencias que tiene sus necesidades de cambio pero que evidentemente hay que valorar hay que poner en valor hay que trabajar con él y hay que llevarlo

a la que creo que merece ser llevado de tal forma que demos pasos para que nuestra sociedad esté orgullosa

de sus medios audiovisuales y sobre todo de sus medios audiovisuales públicos eskerrik asko

señora presidenta señora oregi pues aquí va otra irresponsable

porque yo ya de entrada le digo que voy a apoyar esta iniciativa

no es la primera vez que viene a esta cámara una iniciativa cuestionando la gestión que está realizando la actual dirección de la televisión pública vasca no es la primera vez tampoco

principal responsable como los principales responsables de la que sin duda es la etapa más sombría del ente público

y no es la primera vez que se pide su cese como tampoco es la primera vez de la actitud impasible pasota e irresponsable de este gobierno ante una situación de tanta gravedad porque lo que hoy se debate aquí

pero también la respuesta que una y otra vez ha dado este gobierno la de esconderse y seguir moviendo el árbol desde la sombra y sí señora romero desde la sombra de la ponencia

y se está utilizando como excusa como excusa para una situación que nosotros creemos que es

porque la situación de la señora iturbe es insostenible y lo es desde hace mucho tiempo y creo que ustedes señores del gobierno señores del partido socialista

porque la dimisión se pidió en la legislatura pasada y no solo la pidió este parlamento también lo pidieron los trabajadores del ente también ellos pidieron su cese qué va a hacer el gobierno pues acatar lo que dice el parlamento

o es que los gobiernos no tienen que respetar la voluntad mayoritaria manifestada en este parlamento porque lo que sí ha hecho el gobierno es un desprecio absoluto a este parlamento hacer caso omiso al mandato parlamentario y continuar con la misma dirección

es que en esta legislatura la señora iturbe sigue interinamente y parece que va a seguir interinamente

ley de creación del ente dispone y repasando lo que dijimos en el año dos mil quince para argumentar la petición de cese la verdad es que no es que haya es que hay más motivos que entonces para pedir el cese de la señora iturbe entonces pusimos de manifiesto qué es lo que cabe esperar de e i te be como televisión pública que se paga con el dinero de todos los vascos

que sea un medio de comunicación que recoja los intereses y las inquietudes de los vascos y las vascas de lo que nos preocupa

que cumpla con los compromisos derivados de la ley de creación del ente

firmado con el gobierno vasco y en virtud del cual recibe ciento veinte millónes de euros

que contribuya la difusión del euskera a la difusión de la cultura vasca que suponga un medio de impulso al medio audiovisual vasco y estas cuestiones fundamentales para un servicio público como es e i te be se cumplen claramente no señorías en

en esta cámara hemos debatido en muchas ocasiones sobre los temas tratados en e i te be sobre la pluralidad del ente sobre la objetividad de sus informativos

y los acuerdos también porque luego no se cumplen es verdad es verdad señora romero no se cumplen pero debieran de cumplirse y

hasta el año dos mil treinta y como digo la semana pasada lo presentó la dirección de e i te be y como se dice vulgarmente lo que presentó no tenía un pase presentó un documento de siete páginas

lo fundamental es en contenido en el que era una reiteración de planes anteriores con vaguedades y sin concreción alguna

audiovisual es muy cambiante que el futuro es incierto y que no se pueden hacer previsiones

es que se demostró incapaz se declaró en la comisión de control de e i te be incapaz

y lo puso por escrito porque digo yo que las circunstancias del medio serán las mismas para todas las televisiones

cuáles son las dificultades de la previsión la incapacidad de la actual dirección incapacidad que ha llevado a e i te be con esta dirección a los peores datos de audiencia de su historia

de su plan estratégico incapacidad en la relación con los trabajadores que llevó a esto

radio vasca la primera huelga en la historia del ente incapacidad que ha traído consigo una conflictividad laboral patente con numerosos gastos judiciales

pero es que la cuestión va mucho más allá de la incapacidad e i te be lleva tiempo soportada en una gestión puramente política las decisiones que toma la actual dirección y que toma la señora iturbe son

apartadas de cualquier criterio profesional únicamente sometidas a los criterios políticos del gobierno del pnv y que cuenta con su directora como principal valedora dentro de la casa cualquier decisión que se toma en e i te be previamente

y esa manera de actuar y de proceder es la que nos ha llevado a la situación actual no solo es una cuestión de bajas audiencias que las hay ojalá

los datos están ahí los números dicen lo que dicen pero si el problema de e i te be fuera

la solución sería bien distinta a la que hoy se está planteando en este parlamento pero lo grave lo que aquí analizamos es el dirigismo político

está al frente de e i te be en una coordinación permanente con sabin etxea

tenemos una televisión pública al servicio del nacionalismo gobernante absolutamente entregada a reforzar todos y cada uno de los posicionamientos políticos del nacionalismo esa es la realidad de e i te be y de la gestión

en este parlamento se ha señalado más de una vez la gestión y la manera de actuar de la dirección actual

y aquí no ha pasado absolutamente nada no pasa nada y no pasa nada porque este gobierno y a los partidos que lo apoyan los dos partidos que le apoyan les interesa seguir contando con una radio y televisión pública

pero es que esa manera de gestionar lo público nos está costando mucho dinero

esa realidad sobre las que ustedes no quieren actuar y sobre la que usted ha sobrevolado señora

realmente ninguna respuesta e i te be es un instrumento político al servicio del gobierno

de la estrategia política del nacionalismo gobernante y reforzar única y exclusivamente los mensajes que van en esa dirección

lo que rema a favor del nacionalismo gobernante se eleva a la categoría de noticia lo que no

ofrece una actualidad sesgada interesada la práctica de controlar y de manipular la información está más que asentada en nuestra televisión pública vasca

todo el mundo sabe a qué intereses sirve a los intereses del gobierno e i te be no informa de una manera objetiva y profesional

cada informativo cada programa de actualidad deja clara

que para lo que lo utiliza es para adoctrinar para dirigir

hacia unas determinadas posiciones y esa manipulación es perfectamente constatable en la propia elección de las noticias que se dan en su tratamiento en su presentación no cumple ninguno de los principios básicos a los que están obligadas las televisiones públicas no hay un respeto a la pluralidad hacia la diversidad de pensamiento y que en este mismo parlamento está representada

de cualquier otro en la planificación de los programas no hay espacio para la cultura para el deporte para el entretenimiento no son los contenidos políticos los que priman en e i te be

directa y efectiva llevar adelante los objetivos políticos la cabeza de los responsables de e i te be una programación política eso es lo fundamental en e i te be con objetivos claros y bien definidos servir al nacionalismo

una televisión pública que pagamos todos que nos cuesta mucho dinero a todos los vascos que cuenta con magníficos profesionales pero a los que se aparta

siempre a las productoras amigas y siempre a las mismas una televisión que todo el mundo asume como la televisión del pnv la televisión del nacionalismo gobernante no voy a insistir porque ya lo ha hecho la señora arana una televisión que no está comprometida ni con la igualdad hombres y mujeres ni con la perspectiva de género

no solamente en lo que estamos tratando en la ponencia es necesario un impulso a la profesionalización de la televisión pública

que los actuales donde se premie la capacitación profesional y no el amiguismo político una televisión pública de presentar una programación que refleje la variedad sociológica de los vascos que sea capaz de ofrecer respuestas más allá de lo que políticamente marca el nacionalismo

convencidos de que e i te be puede ser otra cosa y que debe ser otra cosa y que debemos conseguir que sea otra cosa pero desde luego no con la señora iturbe al mando esta dirección no puede seguir al frente y mando de nuestra radio y televisión pública porque sí señora romero sí

otra alternativa otra alternativa de modelo de e i te be y otra alternativa de dirección

su obediencia al nacionalismo y a las posiciones del gobierno vasco es encomiable pero su gestión ha sido pésima y nos tememos que el daño a e i te be pueda ser irreparable y yo creo que las posturas de todos están claros la única es la de eh bildu no sé quién va a salir si el señor urruzuno

o más bien en euskera txapelduna da porque creo que estamos

piensen piensen que otra televisión es posible pero que para eso una nueva dirección es necesaria muchas gracias amaitu mesedez eskerrik asko

esas decisiones responden a tal o cual modelo es cuestión de modelo con este modelo o con el otro

politikoa eso es impulso político

tarte murritzean ba desde una estrategia de acoso y derribo contra e i te be a una estrategia de amparar y de

galdetuen setenta y tres por cientoak

me recupero bien gracias efectivamente no pude acudir por problemas de salud estuvo mi compañero iñigo que me trasladó con mucho gusto lo que allí se habló le recuerdo que sé leer y además me gustan mucho las encuestas sobre todo si son de e i te be

agradecer el voto al pp y me gustaría traerle al eje del mal al lado oscuro

estamos más cerca que nunca de llegar a un hecho histórico y reprobar a una señora

informes de siete páginas a una página por mes y señalar que la enmienda a la totalidad que han presentado el pnv y el pse pues nos parece completamente inútil de filibusterismo más que no es otra cosa que un apoyo explícito a la directora iturbe un apoyo que también tiene que asumir el partido socialista que la pasada legislatura

de e i te be porque ha decidido no hacer nada que desaire al pnv una enmienda

jolín me gustaría saber cuáles son esas medidas necesarias y cuantas sean para hacer garantizar la pluralidad e implicar a los profesionales de la casa en la aceptación de perfiles de trabajo entre otras cosas y lo hacen una semana después de que la señora iturbe viniera a la comisión de control de e i te be a decir que no traía que no traía lo que se le había solicitado hace siete meses me refiero a esas líneas principales de plan estratégico en el que sabían que como todo era muy cambiante como la realidad es gomoide

absolutamente nada pues que quiere que le diga otro brindis al sol

por no hablar de la absoluta falta de concreción sobre las medidas necesarias por no hablar del plazo tan generoso que le dan

de reforma integral del ente qué hablamos de esta legislatura porque si esto incluye la modificación de la ley de creación de e i te be podemos hablar de dos tres cuatro cinco años podemos hacer una porrilla ya le digo yo que hasta dentro de tres cuatro o cinco años más la señora iturbe sigue en su sillón cobrando

no nos extraña absolutamente nada que el pnv haga una decidida defensa de la señora iturbe y de su equipo porque son su equipo

ahí quieren que siga haciendo el trabajo que les ha encomendado al servicio del partido ese es el trabajo que hace la señora iturbe al servicio del partido muy bueno por cierto muy bueno en eso le podemos decir que tiene un diez

mucho del diagnóstico y las soluciones para e i te be hoy se vaya a plegar a esta estrategia y deje pasar la oportunidad de volver a reprobar a una directora que saben que está de sobra que no tiene proyecto

el problema en mayúsculas grande fosforito y con luz

con un proyecto de transición hacia el nuevo modelo que podemos acordar nuestra mano está tendida a todas las formaciones políticas al gobierno vasco no vamos a poner ni un pero pero la señora iturbe está más que demostrado que se tiene que estar fuera y lo que no se puede hacer es esconderse

no se les exige nada nada de nada permítame que les diga que nos parece frustrante y una tremenda irresponsabilidad y supone renunciar a la posibilidad de cambio y de solución lo que hoy elkarrekin

cuyo ciclo hace mucho tiempo que terminó permitir que siga en el cargo

se jubile como ya le he señalado es una irresponsabilidad sobre todo hacia la ciudadanía vasca y para las profesionales de la casa que ambas

vasca que necesita euskadi democrática educativa transparente participativa que cuente con las mujeres y que cumpla fiel y rigurosamente con la función del servicio público a la que se debe como primera tarea señora oregi hablamos del sociómetro me encanta como ya le ha dicho el señor urruzuno la lectura interesada solo de algunos datos del resto de información

lo relegamos a un breve en la web de e i te be curioso

porque como el mismo sociómetro dice el setenta y tres por ciento de las personas encuestadas no la conoce y el ochenta y ocho por ciento no sigue a e i te be en las redes sociales

la más bonita la decoramos con flores y nos olvidamos de todo eso es ocultar información

mucho punto por punto le recomiendo que acuda a la página dieciocho porque no estuve pero lo he leído página dieciocho

objetividad en la información pluralidad y que sea educativa ninguna de las tres cosas cumple y lo puede contractar con la página siguiente en la que las personas encuestadas definen a e i te be como partidista no educativa y no plural

yo creo que no hay mucho más que añadir y también si quiere

valoración de los informativos de e i te be en comparación con otros canales donde como antes se comentaba podrán comprobar

iguales o peores que otras cadenas pues si me lo están comparando con tele cinco o con alguna otra cadena de esa que tanto les gusta a ustedes

y una última recomendación página cuarenta y siete mire si me lo he leído

encontrará que lo que pide la sociedad vasca es que sea un órgano independiente

que no solo elija sino el que controle la acción de la misma le suena porque llevamos
un par de años diciéndolo amaitu termino ya señora romero

en contra de lo que están proponiendo en la radio televisión española yo ahí le daría una vuelta y

venir al lado oscuro eskerrik asko eskerrik asko arana

me gusta más hablar las cosas claras me decía que diera

que no haya hablado claramente no me lo puede decir en ninguna de las ocasiones que he intervenido sobre e i te be

la responsabilidad en este parlamento desde el primer momento que presentó la iniciativa la señora llanos cuando podíamos canalizar ese acuerdo

a favor y hemos mantenido el mismo discurso y lo hemos hecho también dentro de la ponencia hemos trabajado con ustedes con eh bildu con el partido nacionalista con el partido popular con ese objetivo siempre no hemos puesto ni un obstáculo no hemos votado ni una vez en contra de ninguna de las propuestas que se han hecho para trabajar con ese objetivo ni una vez más clara

nosotros no compartimos la gestión el modelo de gestión

lo tanto no me puede decir que no he sido clara yo lo que le estoy diciendo es que imaginen porque como no ha sacado

yo no le he dicho señor urruzuno que ha cambiado de voto porque no se va votar entonces yo no he hablado no me he referido a usted cuando estaba hablando sobre mayorías u opiniones que podían cambiar no lo sé

no se dé por aludido yo todavía entiendo que la segunda intervención habrá oportunidad de que entienda qué es lo que van a votar y por qué lo van a votar

pero vamos a imaginarnos que sí se produce ese cese

y dice que vota a favor de la propuesta de podemos que puede hacerlo por las razones que argumente y con otras yo no voy a hacer que lo cuestione

la mayoría del gobierno porque hay una mayoría también del gobierno no lo asume pero es más

imagínate que lo asume imaginemos que lo asume

qué dejamos a alguien dirigiendo e i te be a la que no le ha dado la confianza a este parlamento esa es la solución para mejorar el servicio público

esa es la solución la solución que compartimos en la radio y televisión pública vasca es una solución

amplia que va desde el órgano de dirección hasta la manera en que se hace la radio y televisión pública vasca y usted lo sabe y precisamente quien ha obstaculizado

el partido popular que efectivamente ha mantenido esa posición aquí

siempre pero no lo ha hecho la radio televisión pública española donde ha tenido que ponerse

para renovar el consejo y usted lo sabe también y usted lo sabe y por lo tanto

ni detrás de una enmienda ni detrás de la ponencia he sido clara y le he dicho qué hacemos dejar a alguien en la que no tenemos

a mí no me gusta ese parche yo quiero hacer la reforma de la ley para que este parlamento con una mayoría cualificada elija cual es esa dirección y cuáles son los parámetros de servicio público que sirven para que esa dirección lo ejecute eso es lo que quiero hacer y hacerlo no solo para una legislatura sino para varias legislaturas y es lo que quiero hacer dentro de la ponencia de la reforma y lo he dicho al principio de la

y lo voy a seguir diciendo y no me escondo decir la verdad y ser transparente no es esconderse lo que no se puede hacer es decir que estás trabajando

dentro de la ponencia y acusar a aquellos que comparten el modelo de reforma contigo de esconderse detrás de la ponencia porque usted sabe que no es cierto usted sabe que no es cierto que no nos hemos escondido nunca no nos hemos escondido nunca ni en privado ni en público porque cuando hemos tenido que hablar de la

lo hemos hecho en público y en privado por lo tanto no lo voy a admitir y señor urruzuno yo creo que yo no le he echado

de lo que va a ocurrir yo no puedo decirle yo he estado leyendo todas sus intervenciones de todas las veces que se ha debatido y qué ha dicho

y en todas compartía un poco el discurso que el problema de e i te be no era solo la dirección

alguna de sus intervenciones que no se solucionaba únicamente con un cambio de dirección que e i te be requería

un cambio estructural para ayudar no solo a la línea editorial a quejarme cuando tratan bien

sino para atender todas las necesidades que hemos venido denunciando dentro y fuera de la ponencia

que es lo que da pluralidad y neutralidad cuando se hacen los informativos desde eso hasta la mejora de la audiencia seguro que apoyando más y mejor a la industria audiovisual es lo que he dicho y por lo tanto ni me escondo

a mí lo que me preocupa y lo vuelvo a decir es qué le vamos a decir a todas esas personas

que apoyen que es una ponencia fallida y que solo sirve para meter a maite iturbe debajo de la ponencia eso se pone en la justificación de la iniciativa

pero lo que no puede hacer después de trabajar en la ponencia es decir a aquellos que queremos seguir trabajando y no compartimos su estrategia

y que tenemos una responsabilidad mayor nuestra responsabilidad déjame que yo

nuestra responsabilidad llega donde llega y se la he descrito desde la anterior legislatura

esa es nuestra responsabilidad y la ejercemos como mejor podemos en este parlamento y fuera de él y yo desde luego a ustedes

no le voy a decir que esa responsabilidad es con una intención

nunca no me lo escuchará espero que no tenga que volvérselo a escuchar a usted de los socialistas vascos gracias

una que usted nos estaba describiendo lo que pasa lo que ha estado pasando con la radio televisión española del pp y dos que está usted muy enfadada con nosotros de acuerdo hasta ahí nos quedamos

señora arana sociómetro efectivamente el sociómetro no son valores absolutos

cómo se hicieron las preguntas o la operativa y se trataba de hacer comparativas estamos haciendo comparativas con el eurobarómetro con datos europeos con datos de otros países con encuestas similares de organismos

que usted no sabe valorar lo que tenemos no sabe no es capaz de reconocer los valores que tiene esta sociedad las instituciones que tenemos

usted hace demagogia hace valoraciones personales totalmente sesgadas

y se va a dar cuenta que está fuera de la realidad que no conoce a la sociedad vasca pero es que no conoce ni a sus votantes entreténgase en leer lo que dicen sus votantes

la e i te be señora arana usted sabe igual que yo y no están escondidos están donde tienen que estar son públicos el sociómetro es público

y ha sido puesto a disposición de todas las personas que quieran baina dena da

a la señora romero la forma tan clara en la que nos ha hecho visualizar los escenarios de futuro los posibles escenarios a los que nos enfrentamos en función

y creo que eso también es importante tenemos que ver no solamente el resultado de la votación de hoy sino cuál es la estrategia de trabajo que tenemos

a partir de ese momento y cuáles son la vías que se abren berriro ere esaten dut

gracias señora presidenta señor urruzuno de verdad yo creo que a usted lo debe contratar de debe de usted ir a donostia al festival de san sebastián

a la lectura de los premios de este año porque de verdad que usted no le puede dar más

de verdad se ha perdido con usted porque ha sido capaz de hacer una intervención en la que

no acabamos yo no acabo de ver creo

no va a votar pero entre el sí y la abstención no lo acabo de ver y la verdad es que mantener ese misterio hasta el final no es fácil ya le digo que yo creo que usted como presentador no tiene precio por lo menos en estos aspectos señora oregi además ya ve la señora oregi se ha dirigido totalmente a usted ahora le tiende la mano al acuerdo ahora que cuando se trata de otras iniciativas como la independencia en los informativos y demás bueno pues entonces ya queda eso para qué ahora para salir del paso y que no

tendemos la mano pero luego ya para qué

señora oregi yo le he dicho muchas veces yo estoy en el parlamento vasco

para exigir que la televisión de aquí funcione como tiene que funcionar yo no estoy enfadada si yo he votado lo mismo siempre

pero si se ha debatido esto como han dicho aquí en cuatro ocasiones hasta en cuatro ocasiones y usted si se da cuenta

sobre la cuestión porque no es capaz porque es que es imposible es imposible defender esta gestión imposible pero no solamente por los datos de audiencia que como le he dicho si solo se tratase de la audiencia teniendo en cuenta que es un servicio público pues casi sería

y es verdad que por cuestiones diferentes

a elkarrekin podemos y nosotros lo tenemos claro hay otros que no lo tienen tan claro pero por cuestiones distintas probablemente con visiones diferentes

y que la dirección de e i te be no se puede mantener y no es una cuestión parcial señora romero no lo es yo comprendo y a ver cómo se lo digo porque le tengo aprecio y porque en muchas cuestiones coincidimos y no quiero que se moleste conmigo pero a ver cómo se lo digo sin

es insostenible y ustedes lo veían igual de insostenible que nosotros y lo siguen viendo igual de insostenible lo siguen viendo igual de insostenible señora romero

el modelo y que qué le vamos a decir a los de la ponencia pues a seguir trabajando para cambiar el modelo es que son dos cosas diferentes que pueden ir en paralelo

pero es que una requiere un trabajo y la otra no admite dilación es que no admite dilación desde la legislatura pasada y es que lejos de mejorar o reconducirse la situación ha ido a peor es que la situación de autocomplacencia va a más

y además la señora oregi hoy ha hecho aquí una intervención

no sabe lo que tiene lo que piensan en e i te be

los nacionalistas y los demás es que no conocen el país que tienen como si en el país solo hubieran nacionalistas

es que no conocen el país que tienen pero mire usted hablaba del euskobarómetro pero si es que hay gente que ha opinado sobre e te be uno y reconoce que no ve

y esta opinando de lo maravillosa y estupenda que es e te be uno después de reconocer que no la ve

ha entrado nunca nunca

y es verdad aquí se habla mucho de la

tiempo para el euskobarómetro decirlo en la propia e i te be

y llevarlo al consejo de administración eso sí con una lectura distinta de lo que los profesionales del sociómetro dieron aquí de la upv dieron aquí porque a preguntas mías

el secreto de las deliberaciones a preguntas mías dijo que había mucho que mejorar y que muchas cosas suspendíamos

en un ejercicio de autocomplacencia que no tiene límites y dijeron que

vamos de sobresaliente en una lectura absolutamente interesada eso sí lo que no dijeron

si pagarían un canon por ver e i te be no lo pagarían no lo pagarían mayoritariamente

y de verdad no lo pagarían cuando debe de ser la televisión y tiene que serlo la más cercana

la que realmente refleje las noticias de aquí la que enseñe la cultura del país el idioma del país tendría que ser una televisión a la que no solamente

e i te be sino hacerlo voluntariamente y no lo harían por qué porque no lo ven así porque no lo ven como un servicio público porque está muy bien eso sí sin verla

de conseguir y es lo que no va a conseguir esta dirección en absoluto es que aunque cueste dinero aunque cueste dinero uno esté dispuesto a ver esa televisión y a pagar por ver esa televisión

no se va a conseguir con la actual dirección por qué porque es absolutamente autocomplaciente porque hace una lectura absolutamente interesada

a su política no a la de los demás porque la cultura está desaparecida porque el euskera está desaparecido porque las mujeres están desaparecidas porque el deporte está desaparecido es
así y es más cuando se le pregunta en ese sociómetro qué quitaría usted amaitu mesedez

política qué es en lo que más horas se emite en e i te be de política y eso es una televisión

y de quién es esa máxima responsabilidad de quién de la dirección de e i te be qué hay que hacer paralelamente trabajar en el modelo y cesar a esta dirección

la televisión de todos y todas las vascas en las que todos nos sintamos reconocidos

sea los vascos y no el pnv muchas gracias eskerrik asko

soy montador de máquina herramienta me quedan dos años en este parlamento y tengo intención de volver a mi fábrica pero bueno si queréis pasarle el informe a la directora del zinemaldi

me lo pienso hasierako

en muchos casos el mal funcionamiento de la administración consiste simplemente en la falta de respuesta y de información o de reacción administrativa tras una denuncia

en otras ocasiones las denuncias ambientales no reciben respuesta debido a la falta de medios técnicos y a la dificultad para comprobar la realidad de los hechos denunciados

dicho sencillamente el retraso en la inspección imposibilita la adecuada comprobación de los hechos e impide el ejercicio de la función de control medio ambiental y posteriormente los procedimientos

no hay planes de vigilancia no hay patrullas caninas no existe especialización de agentes de la autoridad contra el veneno no existe ningún tipo de resolución por parte de la administración ambiental no se adoptan medidas cautelares ni recuperadoras

la consejera de seguridad hablaba de la elaboración de actas medioambientales para facilitar la toma de datos la realización de órdenes de servicio elaboradas anti incendios forestales vertidos en aguas continentales etcétera y que estaban en tramitación otras

etcétera eta berak ere aitortzen zuen que falta coordinar administraciones faltan protocolos de colaboración y coordinación falta mejorar los tiempos de respuesta

eta zer da lortu dena y aquí es un poco donde entramos en la parte de los etxekolanas para verano para empezar pero que esto va a tener un recorrido esperemos que

estamos hablando de reforzar el grupo de delitos medioambientales y potenciar su capacidad de investigación

de los recursos humanos materiales técnicos y formativos necesarios pero no solo

sino también se trata de que se profundice la labor preventiva y que esto llegue a todas las comisarías y que ahí haya formación tanto a los equipos de inspección ocular que se desarrollen protocolos de recogida para las denuncias interpuestas por particulares que es una de las grandes carencias que tenemos que los particulares al final no saben

bien en estas situaciones porque no hay una claridad en la recogida de las denuncias

habla de la creación de una comisión interinstitucional con el objetivo de presentar un plan de actuación

en el plazo de un año en el que se involucrarán además del resto de administraciones implicadas como ayuntamientos diputaciones etcétera los departamentos

colaboración necesaria y esperemos que fructífera a la que evidentemente le haremos seguimiento a esa comisión interinstitucional y también dejamos apuntadas

pueden venir del impulso de este gobierno como puede ser

la ley de agentes medioambientales o el impulso para que haya normas forales también para que se regule la actividad de estos agentes

demandando para que se desarrolle la legislación básica del estado como está desarrollada

con en algunos casos con bastante éxito como en madrid en cataluña etcétera etcétera y finalmente terminamos también

con unas recomendaciones tampoco podemos ir mucho más allá a los ayuntamientos y a las diputaciones para que

en los cuerpos que están destinados a la investigación y a la persecución

para que también ponga los medios humanos materiales formativos etcétera necesarios para que

más eficaces en el futuro por lo tanto bueno el reto queda aquí evidentemente hay mucho por hacer pero creemos que hoy ponemos

un mejor edificio que el que tenemos ahora que esté en mejor dotado y mejor

arratsalde on berriz ere en euskadi hoy solo se sanciona al diez por ciento de las empresas que no cumplen con las leyes medioambientales solo al diez y en euskadi hoy solo se sancionan el veinte por ciento de los vertidos en los que se identifica

o a la empresa responsables solo se sanciona el veinte por ciento de los vertidos y solo se sanciona al diez de las empresas que incumplen esta situación que se da hoy

vulnera el derecho al medioambiente que tienen todas las personas y en su comparecencia el ararteko dijo que este derecho al medioambiente tiene tres componentes fundamentales uno

es el derecho a que la administración actúe y a que las leyes se cumplan y por lo tanto no investigar las infracciones y los delitos medioambientales vulnera el derecho al medioambiente de las personas pero no investigar las infracciones y los delitos medioambientales también conlleva impunidad impunidad que es impensable en otro tipo de delitos pero que sin embargo en los delitos medioambientales sucede eta inpunitatearen aurka jo behar dugu

sabemos cuáles son los problemas sabemos dónde están y tenemos que reconocer que en la persecución de las infracciones y delitos medioambientales hay una dificultad

legal complejo existir una dispersión competencial que no existe en otros ámbitos

tenemos que tener claro que a día de hoy hacen falta muchas cosas que a día de hoy no existen falta sensibilidad en las administraciones faltan medios y falta formación y sobre todo falta cooperación interinstitucional porque hemos hablado mucho de la falta de recursos de la ertzaintza pero tenemos que tener en cuenta que

que los agentes forestales en euskadi supera las ochenta personas que los técnicos de medioambiente en gobierno vasco son más de diez personas en plantilla por lo tanto

se dijo en algunas de las comparecencias y además tenemos a algunos agentes como son los agentes forestales los conocimientos y que sin embargo no se les permite hacer el trabajo como deberían hacerlo a día de hoy por lo tanto sabemos dónde están los problemas y lo que nos falta es una cuestión a la que se refirió la viceconsejera de medioambiente en su comparecencia de una actitud reactiva a una actitud proactiva y yo creo haber percibido algo de este paso de una actitud reactiva a proactiva por ejemplo

en las veces en las que la consejera de seguridad se ha referido a esta cuestión yo le pregunté sobre la unidad de medioambiente en la ertzaintza en mayo de dos mil diecisiete en una pregunta oral y me pareció advertir que

no era así evidentemente luego se han desarrollado diferentes actuaciones y ya en la comparecencia de la propia consejera en la comisión en noviembre de dos mil diecisiete me pareció advertir una actitud mucho más proactiva en reconocer que había cosas que no se estaban haciendo bien y que se podían cambiar y me alegro de ese cambio de actitud egia da egia da

y si hemos sido capaces de escribirlo y si hemos sido capaces de firmarlo entre todos los grupos de esta cámara lo único que nos falta ahora mismo es tener la actitud proactiva suficiente

de poner en marcha estas medidas para que se cumpla la ley para hacer cumplir la ley y acabar con la impunidad gracias eskerrik asko becerra jauna

expresado en esta cámara nuestro interés en que la ertzaintza cuente con una unidad de medioambiente con una autentica

también hemos dicho en esta cámara que esta unidad debe adecuarse a las competencias al modelo policial

y que debe estar en coordinación con la política medioambiental del país vasco además tenemos un modelo el servicio del seprona de la guardia civil un servicio que viene demostrando

un modelo consolidado y un modelo reconocido por su dedicación y por su buen hacer los vemos muy cerca de aquí actuar una unidad en la ertzaintza que podría acomodarse a su estructura y que lo suyo sería crear

al menos inicialmente y claro está con dotación y relación de estructura puestos y funciones esto es lo que nos gustaría

que tarde pero parece que aún no es el momento pero creo que caerá por su propio peso así

en la que se instaba al gobierno a reforzar a consolidar

estructura consolidada que cuente con medios humanos

con suficientes medios técnicos y materiales para desarrollar su labor centrada en la protección del suelo del agua y la atmosfera de la conservación de especies de flora y fauna de la lucha contra los vertidos y la contaminación del medio ambiente

en los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo así como incrementar la colaboración y coordinación con la fiscalía y con las administraciones

con absoluto respeto a sus competencias la iniciativa que hoy se ha acordado es el desarrollo de aquella iniciativa que en el dos mil quince se aprobó

no se ha avanzado y nosotros entendemos que esa unidad debe estar dedicada al delito medioambiental que debe

especializarse en la investigación de los grupos delictivos recogidos en la ley orgánica del código penal y hablamos de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente delitos relativos a la protección de la flora la fauna y animales domésticos delitos relativos a la energía

o de los incendios forestales y los no forestales también es importante la puesta en conocimiento la denuncia la evidencia de una conducta o hecho señalada ante la ertzaintza señalada en el código penal requiere de un procedimiento

requiere de contrastar de ver la gravedad de la misma de encuadrarla en el ámbito penal el atestado y la remisión a fiscalía todo esto hay que

agentes con sus funciones y además dotarles de una formación es verdad que la

en cada comisaría con personal específico para la vigilancia y prevención en zonas

las llamadas patrullas rurales o por lo menos creo que este era su nombre que tienen contacto con el medio natural son conocedores de muchos aspectos en este medio y pueden ser colaboradores en

pero estos agentes que desde nuestro punto de vista hay que tenerlos en cuenta para su colaboración

estos agentes carecen de la formación específica para poder ejercer las labores de indagación de investigación así como formación

en medioambiente estos requerimientos formativos nunca fueron exigidos para los agentes de las patrullas rurales por lo que será necesario ofrecer la adecuada formación para mantener y aprovechar el conocimiento que estos agentes tienen y que es muy importante y por lo tanto creemos que es un valor a tener en cuenta

con los cursos que sean pertinentes para que puedan también colaborar además de una adecuada estructura de agentes en labores de investigación de detección de confección de atestados

creemos que hay una labor importante y ya se ha especificado en los términos en que hemos acordado en la enmienda de transacción

porque entendemos que desde el grupo popular creemos especialmente importante esa relación entre medio ambiente y el departamento de seguridad también las diputaciones forales porque como se ha dicho aquí tienen sus competencias y tienen sus agentes también los ayuntamientos que tienen policía local

formación que llegado un evento pues la capacidad de conocimiento se nota que es

también en amplias competencias en esta gestión y de los recursos naturales por lo tanto señorías

como les decía que habla especialmente de la unidad o reforzar la unidad

el protocolo el plan de actuación vasco y luego como se decía en el punto cuatro en que se insta al gobierno en que durante la presente legislatura en colaboración con las diputaciones forales y respetando el ámbito competencial de cada institución

para que estas y estos profesionales puedan cumplir con sus funciones y sus atribuciones como agentes de la autoridad con la debida eficacia no está mal que

que se desarrolle en esta comunidad autónoma la normativa estatal mediante las oportunas normas creo que necesitamos unos agentes forestales medioambientales

es fundamental básica trasponerla por lo tanto nosotros apoyamos esta enmienda igual que

como a los ayuntamientos para que refuercen el conocimiento la formación necesaria en las plantillas

destinen recursos para que dichas plantillas puedan actuar de la manera más eficaz y eficiente posible

gracias presidenta y buenas tardes a todos en una iniciativa en la que hay unanimidad total y en la que efectivamente ha costado llegar al acuerdo pero hemos sido yo creo todos generosos no voy a

me han precedido en el uso de la palabra ya lo han hecho y en fin está siendo un pleno un tanto intenso y parece que todavía nos queda el último punto es una iniciativa interesante tal y como dijo la

además de necesaria dándole la razón al señor becerra porque es verdad que es un tema que preocupa y en el que hay que meter mano y todavía hay muchas cosas por hacer

en reconocer que probablemente sea una asignatura pendiente aunque como ha dicho el señor otero este llega al parlamento en el año dos mil nueve y con el consejero ares se empezó a andar en este tema aunque probablemente se podía haber hecho más

paso fue importante y también compartimos la importancia que tienen todas las instituciones respetando la realidad competencial que en este tema sí complica la gestión o ha complicado hasta ahora la gestión porque hasta en el caso de la policía

de la ertzaina esto también dificulta a la hora de poner en marcha

que vamos a reclamar a través de la iniciativa el grupo socialista reconoce que hacen falta

por supuesto la necesidad de formación tal y como decía la señora lópez de ocariz en su intervención

no creo que el gobierno ni este ni el anterior ni el anterior haya mirado hacia otro lado permitiendo que los delitos

porque al final los datos hablan si tuviéramos que hablar de esta última legislatura en el dos mil dieciséis hubo diez expedientes sancionadores en el diecisiete se incoan siete expedientes sancionadores y en lo que vamos del dieciocho ya se

que aun no habiendo avanzado como lo vamos a hacer en esta iniciativa creo que sí se toman

le preocupa al gobierno en los dos departamentos fundamentalmente implicados

la necesidad de tomar medidas también se hablaba en aquella comparecencia de la importancia de diferenciar entre la sanción administrativa y el delito ambiental porque es diferente y desde luego el

se quiere tener en cuenta y como digo es importante la coordinación entre los dos departamentos de seguridad y medio ambiente ya aparece en la enmienda que se va a votar

que esos dos departamentos formarán parte de una mesa interinstitucional

sus competencias por otra parte es importante la participación de las instituciones desde los ayuntamientos en los que efectivamente suelen llegar las denuncias

el control es importante son importantes la posibilidad de hacer denuncias desde luego a los particulares tal y como

de poder poner en marcha este tipo de denuncias y las actuaciones del gobierno vasco yo creo que están claras y desde luego es un compromiso uno de los elementos que parecía

en aquellas comparecencias era el papel de la agencia vasca del agua ura fue mencionada en muchas de esas comparecencias

a cauces públicos y también es justo reconocer que ura actúa de la cadena la enmienda a la que hemos sido capaces de

pelos en la gatera creo que es una enmienda ambiciosa que recoge compromisos y desde luego que se marca plazos en un año en el último pleno de control

de cumplimiento de esta iniciativa desde luego lo habremos cumplido el medio ambiente en euskadi estará más protegido quienes pretenden seguir contaminando y delinquiendo con

pero desde luego a la administración hay que ser capaces de darle las herramientas necesarias para también acabar con los delitos medioambientales por tanto creo que hoy damos un avance y desde luego

por unanimidad y también felicito al señor otero por su persistencia porque desde luego llevamos muchos meses trabajando en esto nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo

con la proposición que traemos a debate y con la enmienda transaccionada con pnv se pone encima de la mesa una cuestión urgente la necesidad

la ley estatal de víctimas del terrorismo y hacerlo para que quepan en ella todas las víctimas todas las víctimas y que lo hagan

y a la reparación hoy las víctimas del terrorismo de estado tenemos vetado el derecho a la reparación las víctimas de la violencia de persecución no están reconocidas las víctimas de un delito tan grave como la desaparición tampoco

por la ley todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia un derecho fundamental en un estado democrático no habría más que añadir debería de ser así de simple así de claro es más

no debería ni de existir pero ya lo ven aquí estamos

de que podían solicitar el reconocimiento y la reparación amparada en la ley veintinueve barra dos mil once al ejercitar dichos derechos se encontraron con una negativa del ministerio del interior es cuando tienen conocimiento de que

de la ley de presupuestos generales del estado para el año dos mil trece el gobierno español con mayoría absoluta del partido popular introdujo en el senado

con la que excluía del derecho a la reparación a aquellas víctimas que consideraba que presuntamente pertenecían a una organización terrorista o que supuestamente perpetraron delitos violentos pese a que su culpabilidad nunca

en concreto se hace una interpretación muy particular del artículo ocho punto dos del convenio europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos artículo que establece que se podrá reducir o suprimir

participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos lógicamente en un estado de derecho solo cabe interpretar este precepto desde un prisma garantista es decir en el que solo se es delincuente

así de simple así de claro la presunción de inocencia es un derecho fundamental

por la propia constitución española sino por el convenio europeo de derechos humanos por la carta de los derechos fundamentales de la unión europea y por la declaración universal de los derechos humanos todos ellos quiero recordar tratados

ratificados por el reino de españa pero aun así desgraciadamente a determinadas víctimas se les ha venido negando la reparación se les ha negado no solamente por parte del poder ejecutivo que todos sabemos que pueden atender a plegarse a interpretaciones políticamente intencionadas

se les ha negado también por parte del poder judicial y todo esto no lo digo yo

de la upv ignacio muñagorri en su dictamen sobre indemnización a víctimas del terrorismo denuncia que se trata de una interpretación y cito textualmente

que lo vacía de garantías en relación a derechos fundamentales presupuestos básicos de un estado de derecho constitucional rompiendo con la división de poderes y convirtiéndose el ámbito administrativo

pero muñagorri aun va más allá y concluye que es tal la gravedad de las violaciones de derecho que se han detectado y suficientemente demostrado

de aplicación el delito de prevaricación administrativa del artículo cuatrocientos cuatro del código penal que indica que a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria

se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años asimismo

a falta de decisión legislativa para trasponer

la judicatura legisla y genera incertidumbre es decir el poder judicial legisla

el ejecutivo juzga dice muñagorri qué falta qué será lo siguiente qué el legislativo gobierne lo que evidentemente falta aquí es una verdadera división de poderes y lo que sobra

política sesgada e ilegal al margen de cualquier canon comunitario e internacional me gustaría

vivir en otro como decía no me acuerdo del nombre

me gustaría vivir en otro estado una conquista de la civilización en las democracias avanzadas es la sujeción de los poderes públicos a las normas estatales y convenciones internacionales ahora recuerdo martin luther king y también a los valores que lo sustentan cuando en determinadas ocasiones se arrinconan reglas y derechos básicos aunque ello resulte aplaudido por unos

los poderes públicos deberían ver como se encienden esas luces rojas esas alarmas reflexionar y remarcar

no significa ser débiles sino al contrario fuertes en las convicciones solo así tendremos credibilidad para exigir democracia a otros

pero me gustaría decirles que el artículo veinticuatro de la constitución española dispone que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconoce en conformidad con la declaración universal de derechos humanos y los tratados

me gustaría decirles que el artículo once de la declaración universal

acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías

me gustaría decirles que el artículo cuarenta y ocho de la carta de los derechos fundamentales de la unión europea y del convenio europeo de derechos humanos señala que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad ha sido

en definitiva me hubiera gustado decirles que vivimos en un estado en el que se preservan los derechos fundamentales por encima de las suposiciones pero no ha sido así

sino de que todas las víctimas del terrorismo y digo de todos los terrorismos tengan los mismos derechos de que se les considere víctimas

de que no hay víctimas de primera y de segunda de que las vulneraciones de derechos humanos tengan la misma respuesta de verdad

y reparación y por supuesto garantías de no repetición por cierto garantías de no repetición

aunque ese estado no haya hecho autocrítica ni auto reflexión aunque ese estado no haga nada por investigar aunque se cometa prevaricación administrativa como he mencionado se niegue política y judicialmente la presunción de inocencia es por ello que no nos queda

a las cortes generales la modificación de la ley veintinueve barra dos mil once para regular expresamente que solo se pueda reducir o suprimir la reparación

ha participado en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que haya perpetrado delitos violentos insisto no debería ser necesario pero a la vista está que lo es se sobre entiende pero no

así de claro también pero por favor que legislen las cortes generales

que juzguen los tribunales que gobierne el ejecutivo

todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo

hace falta que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder la separación

se acumule en una persona o grupo de personas de este modo se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos ya que cada uno vigila y controla los excesos de los otros para impedir

que alguno de ellos predomine sobre los demás es la cualidad que caracteriza a la democracia lo somos somos una democracia no me voy a extender mucho más pero no me gustaría terminar

sin hacer una referencia somera al resto de puntos que se tratan hoy y que anunciamos que nuestro grupo parlamentario va a respaldar en su totalidad y más concretamente aplaudimos la iniciativa de instar a los gobiernos vasco y español

a las víctimas que desconocen la verdad e incluso la ubicación de los restos de sus familiares la posibilidad de acceder a toda la información que requieran

con las enmiendas presentadas en el congreso de los diputados a la modificación de la ley de secretos oficiales si no se desclasifica la documentación

la posibilidad de acceder a toda la información que requieren esta reflexión la dejo ahí espero que sirva para algo por último me alegro parece que vuelve a soplar viento a favor de las personas

embarcarse en una singladura de autorreflexión

y en clave de reparación del daño causado y me refiero a la justicia restaurativa la justicia restaurativa

a la que no sería necesaria acudir si existiese una justicia real igualitaria para todos que

respetando el principio de proporcionalidad el principio de legalidad

arbitrariedad porque el estado de derecho no vence no humilla

aplica la ley incorporar la justicia restaurativa

sería aprovechar una buena ola pero no el fin de esta regata aún nos quedan muchas millas reparadoras por surcar

sobre todo teniendo en cuenta las implicaciones comunitarias de la violencia política habrá que explorar también la utilidad

de otro tipo de justicia por eso abogo por la justicia restaurativa una justicia que permita a un mayor número de

de víctimas y a otros agentes sociales y políticos otro tipo de escenarios escenarios como pueden ser

los espacios de diálogo seguros qué espacio de diálogo seguro necesitan ustedes si no es este podemos ir a cualquier lado pero la cuestión es hablar ya no hay armas antes

disuelto eta cuándo vamos a hablar si no se ponen las ideas sobre la mesa y sobre el papel

de igual forma para todas las personas qué tipo de sociedad vamos a construir y con esta reflexión ahí lo dejo pero desde luego me parece que hoy va a ser un día triste no he escuchado al resto de

parlamentarios pero por los intentos de llegar a acuerdo intuyo que hoy va a ser un día triste

para este parlamento eskerrik asko eskerrik asko

terroristas atención integral pero inmediatamente se imponen las excepciones porque hay víctimas otras víctimas porque hay atentados terroristas y otros atentados terroristas porque hay atención pero también inmediatamente hay desatención ese reglamento

sin oportuna transposición una previsión del convenio europeo sobre indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos que en su artículo ocho decía la señora zabala indica que se podrá reducir o suprimir la indemnización la víctima ha participado en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos

según consta en los informes emitidos por la dirección de la guardia civil y la dirección general de la policía de doce y veintiocho de diciembre de dos mil doce respectivamente

honek ezartzen duen delincuencia organizada o pertenencia a una organización que se dedica a perpretar delitos violentos

puntu honetan usted ha mencionado cuestiones que es verdad que dijo el señor muñagorri yo quiero ofrecer también un elenco de vulneraciones de derechos que él presentaba en este dictamen

el principio de legalidad el de seguridad jurídica vulnera la división de poderes y la prohibición de la arbitrariedad resultando que estas denegaciones de reparación a las víctimas resultan ilegales arbitrarias discriminatorias y siendo su aplicación prevaricadora como usted ahora mismo ha dicho porque

que es manifiestamente injusta imagínense ustedes el trato a otras

se hablaría de doble victimación de humillación de insulto a las víctimas bueno pues estas son las circunstancias y en este caso en el que nos ocupa ahora

están condenadas a seguir luchando condenadas a seguir peleando por sus derechos condenadas a seguir reivindicando lo que es suyo condenadas a enfrentarse a la denegación sistemática del ministerio de interior condenadas a defender sus derechos ante la audiencia nacional el tribunal superior o la audiencia

la vía judicial española y ante la imposibilidad de recibir justicia condenadas a acudir al tribunal europeo de derechos humanos y la justicia les llegará

gracias señora presidenta buenas tardes a todos y a todas bueno yo creo que se ha explicado de manera suficiente por la

es verdad que se presentó esta iniciativa fuera de la ponencia la motivación es concreta y está clara a nosotros nos parece

reivindicación justa nosotros entendemos que la ley integral de protección a las víctimas del terrorismo tiene unos objetivos claros la atención integral sobre la base de los principios de legalidad tratamiento igualitario y el pilar que salvaguarda que es la dignidad de las víctimas pues bien la modificación que se hizo en el año dos mil trece creemos que por la puerta de atrás puso en cuestión alguna bases de esa igualdad

que se considera presuntamente pertenecían a una organización terrorista o perpetraron delitos violentos y nosotras las socialistas consideramos que es

en un estado de derecho y que se requiere efectivamente no hablar de presunciones sino de tener una resolución

no teniendo esa resolución judicial firme o no exigiendo esa resolución judicial firme se afecta a la falta de igualdad

de todos los terrorismos es el caso descrito por la señora

es un sufrimiento injustamente causado a los familiares de esas personas afectadas y como le hemos dicho en privado y en público

puntual solicitada en un inicio por el grupo proponente déjenme subrayar que para el grupo socialista es un motivo de satisfacción que en este último debate de este curso parlamentario como resultado un amplio acuerdo aunque no sea total en torno a las víctimas del terrorismo de todos los terrorismos y vulneraciones de derechos es verdad que hoy discutimos en público lo que hoy discutimos en público lo tenemos compartido en un foro más discreto que esta cámara decidió hace año y medio

de esa modificación de la ley y de otras leyes hemos hablado de más propuestas hemos hablado entre nosotros y nos hemos escuchado pero sobre todo debo decir

en esa ponencia también a las víctimas esta en parte se ha decidido hacerla pública trayéndola a este pleno y también ofrece yo creo una parte positiva pues es la ocasión de demostrar

es más efectivo de lo que a algunos les gustaría y que el trabajo en discreción y lealtad mucho más practico que el efectismo

desde un punto de vista inicial a lo mejor la iniciativa era restrictiva el grupo socialista junto al grupo nacionalistas vascos decidimos que

dicha iniciativa con una serie de propuestas que también se han citado y lo hicimos porque a pesar de salir fuera de la ponencia creemos

la verdadera palanca de cambio que debe de estar en el fondo de todas las políticas de memoria y convivencia y siempre lo han sido para nosotras lo fueron

y acordamos también en esta misma fecha otra ley hace diez años en junio

la ley vasca de atención y permítame que pare un momento en ese recuerdo

dando un paso adelante sobre la que regulaba las ayudas que

lo hicimos en un clima político de enorme polarización y división lo hicimos

algunos vaciados cuando intentábamos superar el inmenso dolor del asesinato de isaías carrasco lo hicimos

a las victimas desde los foros y las tribunas mediáticas y políticas

fue posible igual que fue posible entonces es posible ahora seguir mejorando las leyes de atención a las víctimas del terrorismo en aquel momento se aprobó con todos los grupos que estuvieron presente la izquierda abertzale no participo en la votación

puesto una enmienda que se ha incluido en la transaccional en la que se solicita que se ayude y se mitigue la victimización y la carga económica

por lo tanto nos parece recordar lo de antes pero también nos parece importante

lo que hemos hecho desde entonces hasta ahora que han sido cambios también importantes porque desde nuestras diferencias y a pesar de ellas a veces hemos llegado

la del necesario reconocimiento y reparación de las víctimas que nunca debieron serlo porque nunca hubo razón que justificara

se nos recordaba que esta restricción se produjo en el senado por la puerta de atrás igual que se negó la consideración

de la violencia de persecución saben ustedes que hemos sido los y las socialistas bastante insistentes en esta cuestión porque no se trata de contar cuántas víctimas fueron sino que se trata de contar lo que verdaderamente sufrieron

de lo que suponía y supuso la violencia de persecución no se agotaba

para mí fue mucho peor lo que venía añadid el desprestigio y el apartamiento social lo deducía de los rumores de las descalificaciones de los chismorreos de los empujones y de los escupitajos me sentía observada me vaciaron por dentro

me anularon y me cambiaron para siempre la vida cambiaron la mía y con ella la de los míos

algo impreciso separada de tu entorno de tus raíces te sientes condenado a vivir una trágica anomalía de ser extirpado de una sociedad a la que perteneces

nosotros entendemos que el reconocimiento de esas víctimas de la violencia de persecución

no se trata de ser cuantificadas ni contadas han de ser reparadas y reconocidas en los daños que sufrieron

que las víctimas de la violencia de persecución deben tener su lugar

a esas otras víctimas a familias que perdieron a seres queridos y que ni siquiera pueden ir a poner flores en un cementerio ni llorarles ni llorar la heridas n sentir la pena

son las familias de josé humberto fouz fernando quiroga josé juan garcía

o josé miguel etxeberria necesitan saber que paso y donde están sus restos necesitan completar su duelo necesitan saber para poder descansar e incluso diría para poder dormir

ausencia y por último otra voluntad que nos han trasladado también muchas víctimas y que introducimos en la enmienda transaccional que quienes provocaron

digan que siempre estuvo mal y que nunca tuvo razón ni justificación que amparase ese sufrimiento nunca estuvo justificado

que teniendo como eje la protección de las víctimas pueden ayudar mucho a ese reconocimiento del daño causado en definitiva

a lo que teníamos en la agenda los grupos que participamos en la ponencia podríamos haber traído esta propuesta de forma conjunta con el resto de propuestas que es lo que veremos

claro y nítido que son un foco sobre el que llevamos trabajando mucho tiempo y que son el foco sobre el que queremos que se construya la memoria y la convivencia

señorías las víctimas nunca quisieron serla serlo porque no se elige ser víctima la inmensa mayoría además nunca han hecho de su condición de víctimas

las víctimas han recorrido una larga travesía por el desierto en este país desde la nada al reconocimiento mayoritario

las víctimas son muchas y distintas tantas como los sufrimientos injustos que se les causaron y esas víctimas en un amplio consenso

que quieren verdad justicia reparación y memoria

es su gran victoria moral y su particular reconciliación por todo esto

y lo seguirán siendo las víctimas son el espejo que no engaña el que muestra las consecuencias más dramáticas del incontables sufrimiento con el que hemos convivido en nuestro país durante

esa es la razón de que hayamos presentado esa enmienda transaccional de que estemos satisfechos de que vaya a ser aprobada y de que miremos al futuro desde ese acuerdo logrado con la esperanza de que alguna vez sea

lau urte luze eta arazoa konpondu ezean okerrera egin du los derechos de numerosas víctimas del terrorismo están siendo vulnerados por parte del estado en una interpretación no ya restrictiva sino vulneradora de derechos y discriminatoria

profesor muñagorri citado anteriormente en una interpretación ignominiosa falsaria y prevaricadora esta situación ya fue denunciada en la comisión de derechos humanos de este parlamento en abril del año dos mil catorce con motivo como decía de la presentación del informe de la cátedra de derecho penal de la upv

esta situación no solo no ha sido resuelta sino que se ha visto agravada y si no fuera por la doble victimización que esta actuación del gobierno de españa está provocando en numerosas víctimas por el sufrimiento añadido incluso por el quebrando económico real que les está ocasionando

de las conclusiones de la ponencia memoria y convivencia ese era nuestro deseo

era no tener que reclamar la modificación de la ley de víctimas del terrorismo nuestro deseo era que el gobierno español corrigiese motu propio esta actuación injustificable la realidad ha sido otra la realidad es que han pasado cuatro años y seguimos igual igual de mal y por lo tanto peor espero que el nuevo tiempo abierto en el estado sirva también para corregir esta situación discriminatoria e injusta espero

de memoria y convivencia seamos capaces de acordar unas bases sólidas sobre las que construir la convivencia futura nuestra determinación es alcanzar un acuerdo que basado en el reconocimiento de lo injusto y el sufrimiento causado a tantas víctimas nos permita compartir políticas

en materia de memoria convivencia y derechos humanos porque todas las víctimas merecen todo de nuestra parte nuestro compromiso es contribuir a conseguirlo cuanto antes mejor

más o menos estamos hablando de una cuestión

de aplicación de las leyes que tienen decisiones administrativas en un caso y que también la aplicación de las leyes provoca decisiones judiciales

las leyes y las decisiones que emanan de esas leyes pero que están ahí y que forman parte del ordenamiento jurídico y de la aplicación del ordenamiento jurídico y eso puede tener alternativas el texto tal y como lo plantean

no lo puede aprobar vamos a hacer un planteamiento de ubicación de la iniciativa donde corresponde desde nuestro punto de vista y ello por tres razones primero consideramos que no es el lugar

una proposición no de ley en el parlamento vasco pidiendo la reforma de una ley de otro parlamento es el congreso de los diputados

cuestiones como la que ustedes plantean podría presentarse aquí una iniciativa

si no hubiese otras vías en relación con el cambio

del ordenamiento jurídico que tenemos y podríamos hablar de esas cuestiones pero hay posibilidades de hablar de la reforma

en el congreso de los diputados miren la ley veintinueve barra dos mil once de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo fue

democrático fruto además de un gran acuerdo una ley del congreso y es ahí

pero donde se puede hablar de su virtualidad de su vigencia de sus necesidades de sus carencias está bien claro

y señora zabala usted ha dicho que hay que actualizarla

tienen instrumentos algunos de sus compañeros de ponencia parece que les sugerían el trabajo en la misma pero y segunda razón todos ustedes firmantes de esta iniciativa o que van apoyar esta iniciativa

donde pueden llevar a cabo la modificación de la normativa vigente al ser hoy de ese ámbito normativo no solo grupos parlamentarios

un gobierno que también puede tener iniciativa legislativa para aprobar proyectos de ley de modificación de las leyes en relación con esta cuestión

y además todos ustedes firmantes de esta iniciativa además han construido una mayoría política en el congreso de los diputados que pueden también expresarse

parlamentaria y no cabe ninguna duda de que

parlamentario también trabajará por aprobar cualquier modificación que mejore cualquier ley si hay un planteamiento como pasa

de la modificación de las necesidades de las oportunidades de las carencias

y habrá desde luego en ese ámbito cuestiones importantes que puedan ser planteadas

como hemos dicho del gobierno vía proyecto de ley o vía enmiendas

veintinueve barra dos mil once pero habrá que plantearlas allí en las cortes y someter el debate allí a un análisis de forma y de fondo

trámite de esta proposición no de ley que no reforma la ley

nosotros votaremos en contra de la iniciativa por una cuestión como la que he explicado fundamentalmente

no podemos regular y para qué vamos a instar cuando hay legitimidad para impulsar este debate en las cortes generales en el congreso de los diputados mejor instancia para pedir una regulación normativa que una iniciativa legislativa no existe

donde se puede y donde se reforman las leyes este tipo de leyes a las que nos estamos refiriendo por eso

al señor pablo iglesias o al señor esteban o

o al señor presidente sánchez habrá que pedirles

me parece que me lo comentarán en la réplica porque como estoy hablando del trámite en las cortes generales en la réplica me hablarán de que sí que ya tienen firmada

para articular esas iniciativas y para impulsar ese debate parlamentario

les habrán pedido ustedes mismos que formulen la iniciativa que corresponda

por parte de los grupos un proyecto ley por parte del gobierno está claro para reformar la ley veintinueve barra dos mil once o sea que han mantenido algún contacto en ese sentido con el actual gobierno de españa con el señor presidente del gobierno con el ministro de interior o con los grupos parlamentarios para forjar una iniciativa parlamentaria

lo dirán porque por una pnl no reforman las leyes por una proposición no de ley no reforman las leyes lo reforman iniciativas legislativas

hay cuestiones difíciles cómo se acredita por resolución judicial

que un terrorista que fallece digo en ámbito general de lo que puede ser una interpretación del punto primero que fallece por manipulación de una bomba en un atentado terrorista por un enfrentamiento con la policía por un atentado suicida yihadista

por esas razones o por razones de su pertenencia a esa banda es decir estos terroristas que han participado en esos atentados no han sido juzgados pero a una organización terrorista pueden ser reconocidos en algún momento como víctima hay algún resquicio cómo regulamos eso

o de eso podríamos hablar en algún debate parlamentario

ya sabemos pero alguna forma habrá de analizar esos casos concretos en la formulación legal que se puede plantear donde corresponda

el gal y eso está claro y habrá que regular su caso pero no aquí ese crimen o crímenes similares

será a través de un debate jurídico político normativo en el congreso de los diputados análisis de la reforma legislativa y además dentro de lo que es la aplicación de las leyes en las que nos basamos hay decisiones

que se fundamentan en resoluciones administrativas o en investigaciones policiales que también pueden tener efectos jurídicos es decir las resoluciones judiciales las tienen pero las resoluciones administrativas o las investigaciones policiales las resoluciones policiales

efectos jurídicos mire sin ir más lejos muchos de ustedes en la ley doce barra dos mil dieciséis

han establecido solamente trámites administrativos

o sea que a veces resoluciones administrativas pueden tener efectos y si ustedes mismos lo han reconocido en el trámite de aprobación de la ley

es cierto que no solamente en cuestiones como estas la resolución judicial es exclusiva puede haber puede haber otro tipo de resoluciones

de la propuesta de transacción presentada y mi grupo votará en contra por el hecho de que la reforma de la ley veintinueve barra dos mil once no corresponde a esta cámara y sí al congreso donde todos ustedes tienen representación

y por otro lado porque se habla de cuestiones en el resto de puntos que están contempladas

y que se pueden ejercer se pueden aplicar se pueden cambiar y se pueden exigir también a los tribunales en relación con las cuestiones que ustedes han planteado

pero esto no es un debate de ideas esto es una cuestión de realidades y de aplicación de la norma jurídica y de los procedimientos de regulación

para cambiar los procedimientos de regulación y las normas jurídicas muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria

lege hau han aldatu behar delako y lo que sí les quiero explicar es un poco el calvario que han tenido que padecer todas estas personas

el amparo en el constitucional víctimas del gal interpusimos recurso ante el tribunal europeo de derechos humanos

en tela de juicio que no era creíble la lesión de la presunción de inocencia la gran mayoría de los diversos juristas consultados

daría la razón a las familias recurrentes pues no ha sido así en la mayoría de los casos estrasburgo ha inadmitido a trámite estos recursos

el caso es que demandas perdón el caso es que muchas han sido inadmitidas a trámite

paso el siguiente paso es presentar un escrito en el consejo europeo de derechos humanos dependiendo de la onu

no tienes ningún tipo de derecho a recurrir entonces si ya no es suficiente tener que haber atravesado todos los tribunales

para que también allí nos inadmitan y usted dice muy a la ligera me parece a mí que esto hay que llevarlo

pero me hubiera gustado que ustedes hubiesen apoyado y por lo menos si no

lo que no acepto es un no un no sabiendo el sufrimiento que todas estas personas han tenido que padecer el sufrimiento que todas estas personas

judicial insidioso que ustedes les han introducido y digo ustedes han introducido porque

fue una ley que fue aprobada por la mayoría del partido popular

ese tipo de leyes de modificaciones de la ley

y eso no se puede hacer en un estado democrático de derecho

en una conversación privada le dije que me alegraría me alegraría mucho si es que apoyasen esta iniciativa y sí he dicho que estoy triste y es verdad

me voy a quedar con lo positivo y lo positivo es el acuerdo al que hemos llegado las personas que estamos presentes en la ponencia pero el señor alonso no está aquí y el señor alonso sabe que le podía sacar los colores

y lo podría pero lo que yo sí pido es una segunda oportunidad y sigo tendiendo la mano y sigo tendiendo la mano y espero que en madrid cuando llevemos

ustedes como partido popular tengan la calidad humana de reflexionar sobre esta iniciativa es más

aún espera y desea y necesita ver ese pp del país vasco que por ejemplo de la mano de iñaki oiarzabal planteaba en el senado

e inaplazable de los poderes públicos de garantizar las políticas que expresen

reparación y justicia debido a las víctimas del terrorismo y de vulneraciones de derechos humanos

y los que pudieran provocárseles y adoptando las medidas que eviten su ofensa humillación y revictimización hoy hubiera sido una buena ocasión para que se diera también el consenso casi unánime que suscitó su iniciativa en la cámara alta

porque tienen mucho mucho margen de mejora para que demos pasos juntos y juntas porque queremos contar con ustedes

porque a pesar de lo ocurrido quisiera confiar porque les va a ir mejor

porque ahora solo tenemos la palabra porque debemos hablar ponentziara memoria eta bizikidetza ponentziara etorri

desconocimiento o por falta de argumentos ciertamente hoy usted tiene un papelón terrible ciertamente lo tuvo

interponer absolutamente ni un argumento pero lo que le solicito es que no desvíe la atención no estamos hablando de bombas que estallan accidentalmente fortuitamente no estamos hablando de muertos a enfrentamientos ni tan siquiera estamos hablando de esos muertos mal llamados policiales todas estas víctimas todas estas víctimas fueron por asesinatos muchos de ellos la mayoría sin esclarecer todos ellos asesinatos imputados a organizaciones de terrorismo de estado esas son las víctimas a las cuales ustedes quieren discriminadas

de legalidad no es una cuestión de procedimientos es una cuestión de lo que se quiera hacer con las leyes de lo que ustedes han querido hacer de reparación de víctimas del terrorismo no es una cuestión de competencias no es una cuestión de dónde se hace el debate si se hace aquí si se hace en la ponencia si se hace en cortes es una cuestión de posición política y la posición política que ustedes defienden aquí es

porque hacen del no reconocimiento de la denegación de ciertas víctimas posición política porque hacen del trato discriminatorio del trato arbitrario a algunas víctimas posición política y eso me parece vergonzoso les tengo que decir que ni es nuevo ni es incoherente efectivamente porque me acuerdo de unas declaraciones en este mismo atril del señor antonio basagoiti qué lejos queda

eta asesinó a ochocientos cincuenta y seis personas quien defendemos la unidad de españa

cero y no es un error de cálculo es ese precisamente su relato es ese precisamente el relato que quiere imponer con la utilización absolutamente arbitraria y torticera de esta entre otras de esta ley y es eso lo que estamos viendo que para ustedes no hay más víctimas

esa es su posición ajena a la verdad al principio de realidad es esa la posición que absolutamente no le compra nadie y por eso ustedes hoy

gracias señora presidenta buenas tardes de nuevo yo quiero lo he dicho desde el primer momento en la ponencia de memoria y convivencia

hemos estado hablando de muchísimas iniciativas algunas se refieren a esta ley que

no pero todas ellas tienen que ver con la memoria y la convivencia de nuestro país

se construye día a día y se construye aquí y allá

esos foros tenemos que estar todos y todas y permítame que diga que también espero que esté el partido popular efectivamente esa modificación de ley se tiene que hacer en el congreso de los diputados sabemos todos y todas

pero en esa modificación de ley como en todas las modificaciones de ley que afecten a la memoria y a la convivencia y a solucionar

de todos y todas los que lo hemos sufrido necesitamos todos señor barrio también necesitamos la colaboración y el trabajo aquí y allí del partido popular porque usted sabe y usted conoce

de lo que es la construcción del futuro de euskadi porque muchos y muchas de sus compañeras han sufrido y han sido víctimas y esta ley las atendió como la ley vasca también las atendió y se les echa en falta

en la que podamos sentirnos cómplices y participes de una sociedad más decente que de verdad se crea el que nunca estuvo justificado debe contar con la participación de todos no es cuestión del presidente sánchez no es cuestión del lehendakari

la responsabilidad sobre las víctimas de todas las víctimas sin equiparaciones pero sin exclusiones

porque todo el país sufrió con ella lo que fue un auténtico calvario de la ciudadanía y de la sociedad vasca por lo tanto no importa el foro y no importa el que importa que es ellas las víctimas sean las protagonistas

y que la responsabilidad sea de todas no podemos dejar a nadie fuera lo decíamos antes con las víctimas del franquismo yo

lo digo con todas las víctimas de todos los terrorismos y de vulneraciones de los derechos humanos en la lucha por la memoria de estas víctimas y por sus derechos
no sobra nadie más bien sigue faltando gente muchas gracias eskerrik asko romero

bien brevemente señora presidenta gracias mire señora zabala al final usted me ha dado la razón cuando ha hecho justo

acudir allá y ver desestimadas algunas pretensiones no es un problema del partido popular ni del gobierno de españa son las decisiones judiciales basadas en las leyes eso es lo que usted ha puesto de manifiesto y lo que yo digo que es lo que hay es decir el tribunal europeo de derechos humanos inadmite porque aplica la legislación española presenta una proposición no de ley así que no puede cambiar nada vuelvo a decir establezca

sobre qué cauces sobre qué medidas qué instrumentos están aplicando están llevando a cabo como iniciativa legislativa en las cortes generales nadie

el tribunal constitucional o tribunal europeo de derechos humanos pues aplica la legislación vigente legislación que se puede cambiar o que se puede ampliar o que se puede mejorar y ese es

y desde luego yo sí que recojo lo que usted ha planteado que reflexionaremos claro que reflexionaremos señora zabala si hay una iniciativa legislativa por supuesto si hay una iniciativa legislativa se habla de la reforma

de víctimas para mejorarla para mejorar procedimientos establecer cuestiones que no han quedado claras o que no están claras o que se han visto que se identifican mal en los tribunales pues claro que trabajaremos trabajaremos entre todos

y desde luego enmendaremos o trataremos de ver cómo algunas situaciones se pueden arreglar pero a día de hoy

están ahí se pueden cambiar las leyes provocan decisiones judiciales o decisiones administrativas

y que en aplicación de las leyes también se pueden perder o no pueden prosperar

en una cuestión de forma en relación con este debate que usted nos ha planteado aquí

de la enmienda de transacción en relación con las iniciativas legislativas o con el gobierno de españa en relación con esta cuestión

nadie me lo ha dicho bueno pero lo veré con atención y desde luego

constructivos y aportaremos en el debate legislativo y señora romero

y es porque nosotros entre otros pero nosotros hemos sido víctimas de persecución y compañeros de víctimas

del terrorismo precisamente de la estrategia política de la que no se desmarca

lecciones las lecciones en la boca

son el mayor sarcasmo desde luego en relación con la situación que él defiende en relación con los postulados en los que él se enroca y esa es la situación y por eso nuestra participación en una ponencia de estas características

todavía no se ha desmarcado de los crímenes de eta no los ha condenado y en ese sentido

asignatura pendiente que tiene la propia ponencia en la que usted trabaja el señor muñagorri al que han

intervenido compareció en esta comisión y habló señor

profesor mío de derecho penal en la facultad de derecho de san sebastián

pero yo no tenía que debatir con el señor muñagorri yo no tenía que debatir con el señor muñagorri en una comparecencia de un compareciente podría preguntar o podría escuchar o podría tomar nota de lo que dice

en esta clase suya de manipulación usted me decía que yo

que usted participaba usted estaba de acuerdo y yo no pero yo no tenía que debatir allá con él él venía a plantear y desde luego

en aquel momento con él quiero decir porque bueno además un catedrático de derecho es posible que yo aunque

compareció tomé nota y desde luego dijo más cosas de las que usted le interesaban también en relación con el reconocimiento y con la aplicación de las leyes

hagan una reflexión ustedes también planteen este tema busquen un acuerdo busquen las mayorías hagan una reflexión seria en relación con la mejora de la ley

a hacer ese análisis pero desde luego yo creo que también

hauei aditzen diegu beren kabuz dihardute publikoki jóvenes lesbianas gays transexuales bisexuales

se movilizan y disfrutan con orgullo y sin drama lamentablemente también tenemos que hablar

en los cuales realizan operaciones de limpieza preventiva o de cómo todavía

está castigado con pena de muerte y en decenas de ellos con prisión que puede ser hasta cadena perpetua o incluso

muchos estados se imponen multas trabajos forzados o deportaciones

ha tenido como respuesta la expulsión de una cafetería o la agresión que sufrieron una pareja de chicas del mismo queremos recordar la violencia que se está ejerciendo en varios puntos del estado contra los hombres y mujeres transexuales especialmente contras estas últimas

el hecho de que la transexualidad hasta hace pocos días siguiera estando catalogada dentro de los manuales de trastornos psiquiátricos tanto por la oms como por la sin que exista ningún razonamiento científico para que esto fuera así este hecho que problematiza

esperamos que estos pasos sirvan para ir avanzando en la normalización y en la atención adecuada que merece el colectivo y todo esto

efectivamente la violencia se ejerce contra el colectivo pero todas las personas sufrimos las consecuencias de vivir en un mundo en el que esto sucede